duguna gazteleraz irakurriko dut el parlamento vasco

de intervenciones quirúrgicas practicadas en distintos centros sanitarios tanto públicos como privados de nuestra comunidad autónoma asimismo

de que se garantice el cumplimiento de los procedimientos legales para compensar así a todas las ciudadanas y ciudadanos afectados en ese sentido una vez identificadas las personas afectadas instamos a osakidetza

de responsabilidad patrimonial incoados en relación con dichas operaciones quirúrgicas

de concretar las responsabilidades existentes y poder proceder a compensarlas lo antes posible asimismo

para poder llegar a acuerdos que satisfagan a las personas afectadas y a que se les facilite la información

necesario durante todo el procedimiento además instamos

a que continúe con las diligencias de investigación necesarias para esclarecer lo sucedido y poder adoptar las correspondientes medidas como en su caso emprender acciones legales contra la empresa farmacéutica que suministró

así como aquellas otras relacionadas con los protocolos de mejora de las medidas de seguridad y las prácticas clínicas para evitar que se produzcan en el futuro

presidenta buenas tardes miembros del gobierno señoras y señores parlamentarios brevísimamente

que ser un compromiso de los partidos y de osakidetza

el esfuerzo que hemos podido hacer más o menos pues tiene que dar este fruto necesariamente agradecer también la iniciativa

de referencias desde el parlamento vasco mucho mejor en relación con una cuestión como esta

la enmienda de transacción y efectivamente pues que nosotros vamos a votar a favor y efectivamente

en primer lugar como no puede ser de otra manera la solidaridad desde este parlamento

esa pérdida de visión esas deficiencias esos errores eso que todavía pues queda por dilucidar definitivamente en relación con las

practicadas en diferentes centros sanitarios hay que decirlo así centros de osakidetza y centros que no son de osakidetza como también hay que recordar que

parece ser afectados en la comunidad autónoma vasca sino también hay cuarenta y uno afectados en otras comunidades autónomas por ahí están los datos y las comunidades autónomas andalucía aragón canarias extremadura

han sufrido y su sanidad pública y su sanidad privada precisamente y sobre todo los afectados cuarenta y uno personas en principio estas intervenciones quirúrgicas practicadas deficientemente el compromiso desde luego del parlamento de llevar a cabo ese seguimiento del caso pues hace que efectivamente

los miembros de la comisión de salud del parlamento vasco sin duda estaremos pendientes de toda está cuestión está claro que en ese sentido una vez identificadas esas personas

que tramite los procedimientos de responsabilidad patrimonial es lógico

que lo tenga que hacer hay responsabilidades seguramente y en ese sentido valoramos también que

pretendíamos en la enmienda de totalidad se hable de ese proceso de diálogo

a partir de la información y del asesoramiento y de las responsabilidades y de las reclamaciones pues también

esas diligencias de investigación parece que todavía quedan cuestiones por dilucidar en relación

intervenciones bueno pues vamos a conocer al máximo precisamente para luego actuar convenientemente con la ley en la mano en esta cuestión y dar satisfacción desde luego

está trabajando hay una línea de investigación la situación actual es que se está realizado en coordinación además con las comunidades autónomas

clínica con los profesionales sanitarios que han utilizado el producto

con los profesionales que han notificado los incidentes también se ha enviado una encuesta a través de las comunidades autónomas a los centros españoles

sobre el comportamiento del mismo se están analizando los resultados de esa encuesta también una investigación analítica se han enviado muestras

en valladolid para realizar análisis químicos y toxicológicos esta línea de investigación se realiza además en coordinación y eso lo dice la agencia española del medicamento y productos sanitarios con el gobierno vasco

también hay una línea de investigación técnica de la agencia española del medicamento y productos sanitarios ha mantenido reuniones con la empresa fabricante que es alemana

está recopilando documentación sobre el proceso de fabricación y los controles efectuados la investigación que está llevando a cabo el fabricante sobre los casos españoles se ha requerido a la empresa alemana la realización de exámenes químicos físicos y toxicológicos y la agencia española del medicamento y productos sanitarios está valorando los resultados y desde luego esa es la cuestión

lo que hemos aprobado es importante tiene que dar garantías tiene que dar a los afectados y hay que asumir las responsabilidades y hacerlo con la ley en la mano pero desde luego con el realismo que un tema como este conlleva muchas gracias

gracias señora presidenta buenas tardes a todos señorías cuarenta y uno afectados por

en españa en las diferentes comunidades autónomas de los cuales trece en el país vasco

uno en cruces y cuatro en algún centro privado eso

la similitud de los casos con estos efectos adversos se denunció se comunicó a la agencia española del medicamento que inmediatamente

la dispensación de este producto además de los casos conocidos en las diferentes comunidades autónomas y en euskadi también hay casos

y finalmente incluso en inglaterra por lo tanto hay un factor común que es un producto que por cierto lleva veinte años ya utilizándose

pero ha habido alguna modificación de este producto en la fabricación

en la dispensación en fin estas son preguntas que se hacen los investigadores no solo análisis químicos y toxicológicos sino también sobre este otro tipo de elementos de la cadena

en fin el gobierno vasco efectivamente como es su obligación tenido en su caso y como responsable ocho casos en su haber pues efectivamente debe de interesarse para estudiar

responsabilidad objetiva es quien ha puesto los hospitales donde se han producido los casos quien ha proporcionado los médicos

con una serie de efectos adversos por lo tanto le toca intervenir le toca estudiar qué ha pasado y ver responsabilidades propias y ajenas y cuando estas responsabilidades estén depuradas exigir efectivamente las consecuencias que se deriven

mientras tanto con los damnificados efectivamente hay una tarea que realizar que ya se ha mencionado aquí solidaridad por parte de todo el parlamento también de nuestro grupo parlamentario

y sobre las medidas a las que se pueden acoger asesoría también para que ellos puedan participar en las reclamaciones porque las reclamaciones

en fin como décimos intervenciones que ya se han puesto en marcha y que desde aquí queremos continuar impulsando y apoyando

todos los pasos de la cadena dónde está el problema y exigir las responsabilidades que correspondan nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea

únicamente para decir que votaré a favor de la transaccional habíamos presentado una enmienda de totalidad entiendo que todo lo que planteábamos en esta enmienda de totalidad

y efectivamente como se ha dicho se trata de pasar ahora de las palabras a los hechos

atenderles informarles y corregir todo lo que se haya hecho mal en fin el acuerdo saldrá por unanimidad creo que es una buena noticia y esperamos que sirva para algo

por lo tanto en primer lugar en nombre de nuestro grupo parlamentario me gustaría solidarizarnos con todas esas personas que han perdido la visión de un ojo

eta horregatik uste dugu egokia dela hau ere jasotzea erdibidekoan y creo que es importante volver a subrayar que todos los grupos parlamentarios el lehendakari el gobierno vasco y especialmente el consejero de salud y el resto de responsables del departamento

así como las y los profesionales del servicio de oftalmología la dirección médica del hospital universitario donostia de basurto

todas y todos estamos preocupados por lo ocurrido queremos encontrar la mejor solución a esta situación y en ese sentido

y se siga ofreciendo el máximo apoyo de forma personalizada porque tampoco vamos a olvidar que fueron los propios facultativos del servicio de oftalmología del hospital universitario donostia

y manifestaron su sospecha del defectuoso producto sanitario

no podemos olvidar tampoco que gracias a esa rápida actuación se han evitado más casos tanto en euskadi como en otras comunidades autónomas e incluso

que es necesario investigar lo sucedido y poder esclarecer las causas las razones los fallos

esas diligencias ya se han iniciado y como sabemos el propio consejero de salud ya dijo que incluso se había enviado una muestra del lote del producto

no tenemos ninguna duda de que todas estas investigaciones ayudarán a esclarecer mejor los hechos y que servirá para poder adoptar las medidas oportunas de cara al futuro pero además los resultados de esos análisis van a estar a disposición del resto de todos los pacientes afectados también los de los centros privados

para defender una iniciativa del partido popular en relación a que el gobierno vasco elabore un plan especial de empleo dirigido a las

en álava consideramos que esta iniciativa desde luego es absolutamente

que municipios del territorio histórico de álava en donde hay unas altas tasas de desempleo superiores al veinte por ciento se han quedado fuera del programa de estas ayudas

de estas ayudas tiene su base en una orden de la consejera de competitividad y desarrollo económico que se aprueba a finales de junio

me da pena que el lehendakari se vaya en este momento pero bueno y que no haya ningún miembro del gobierno pero bueno a lo largo de mi intervención igual tengo algo de suerte y llega alguien más que nada porque le instamos directamente al gobierno a una cuestión

lo va a entender también o lo ha entendido el resto de la cámara decía que este programa de ayudas el programa se basa en una orden de la consejera de desarrollo económico y competitividad del veintiocho de julio del dos mil quince

generadora de empleo para impulso de las zonas de la margen izquierda ría nervión y oiartzunaldea es lo que se conoce como el programa

este programa se encuadra dentro de un mapa de ayudas regionales que fue aprobada por la comisión europea en el año dos mil catorce para la concesión de incentivos regionales para la promoción de la inversión empresarial por lo tanto el objetivo de este programa es incentivar la inversión productiva la generación de empleo es un programa que va directamente vinculado a la generación de empleo programa honen ardatz nagusia da enplegua

laguntza batzuen ondorioz este programa se basa en la discriminación positiva ya que se destina a zonas especialmente desfavorecidas

las que tienen una alta tasa de desempleo la dotación del programa son ocho millónes de euros son subvenciones no reintegrables

de la inversión la curiosidad y ha sido el motivo de la presentación de esta iniciativa es que

han quedado excluidos municipios del territorio alavés como señalaba anteriormente tienen importantes tasas de desempleo tasas de desempleo superiores al veinte

se puede beneficiar de estas ayudas sí en cambio municipios que estén radicados en la margen izquierda en concreto siete ayuntamientos y sí municipios que están

once municipios todos creo que compartimos la necesidad de que en un momento

de la incipiente recuperación económica con el objeto de consolidar la misma es necesario medidas que incidan directamente en la creación de empleo y en el apoyo a la competitividad de nuestras empresas y eso se tiene que traducir

en las que las tasas de desempleo son mayores como decía municipios de álava se han quedado fuera en concreto municipios como llodio amurrio salvatierra oyón donde las tasas

al veinte por ciento y a nadie también poco se le escapa no solo a los que somos alaveses sino que creo también es una cuestióncompartida por los parlamentarios de territorios vecinos que álava presenta y estos municipios concretos radicados en territorio alavés presentan unas características propias de acuerdo a su demografía y a su geografía es decir peculiaridades geográficas y demográficas que hacen que la recuperación

en otras zonas y especialmente en comparación con otros municipios radicados en los territorios vecinos que por cierto sí tienen ayudas

por lo tanto a este hecho se une lo que he dicho anteriormente que del programa indartu se quedan fuera las estén radicadas en territorio alavés y que incluso estos municipios que he señalado tienen tasas de desempleo mucho mayores los municipios que han recibido o que pueden recibir ayudas al amparo de este programa por todo ello teniendo en cuenta que a día de hoy no se ha adoptado ninguna medida por parte del gobierno vasco que es la institución competente porque tiene la competencia en materia de políticas activas de empleo y también

teniendo en cuenta que no se ha diseñado por parte del gobierno vasco ningún plan específico que pueda compensar a la comarca al territorio alavés y especialmente a estos municipios teniendo en cuenta también lo que he señalado de la especial situación demográfica y geográfica de estas zonas alavesas

de devolución de doscientos veinticuatro millónes euros por las vacaciones fiscales teniendo también en cuenta

en álava en relación con los tres territorios y teniendo también en cuenta las comparecencias recientemente de los presupuestos en donde al consejero de empleo y políticas sociales que también lamento que no pueda

en este debate imagino que tendrá cuestiones más urgentes que atender porque siempre suele estar en los debates en este parlamento digo decía que teniendo en cuenta que

cuestión nos dijo que no había un plan específico para las zonas más desfavorecidas del territorio histórico alavés hemos considerado conveniente plantear esta iniciativa para su debate en esta cámara y sobretodo que creo que cobra más actualidad cuando vemos que no hay una plasmación

zonas y teniendo en cuenta que han quedado excluidas del programa al que hacía referencia creemos desde el partido popular que hay una clara discriminación hacia los municipios que he señalado anteriormente que tienen esas tasas de desempleo incluso mayores que los municipios que

verse beneficiados por estas ayudas y en ese sentido instamos al gobierno vasco a que proceda a la creación de un programa especial de apoyo a la generación de empleo en las zonas desfavorecidas de álava en colaboración con la diputación foral de álava especialmente vinculado al desarrollo local de las cuadrillas y municipios

de todos los grupos este acuerdo va a salir por unanimidad en esta cámara

compartida y ahora solo lo que queda es que este gobierno del que no hay ningún representante en este momento se ponga manos a la obra y más pronto que tarde veamos ese plan

a las zonas desfavorecidas de álava porque creemos que es necesario y que desde luego paliaría o subsanaría la situación en la que se han encontrado

histórico de álava que ha sido excluido de las ayudas que se contemplan en el programa

y estaremos atentos a ver si el gobierno vasco cumple

herri batzuk araba también tiene zonas en las que el porcentaje de desempleo es preocupante aiaraldea agurain

en aiaraldea laudio diecisiete coma nueve por ciento de paro del cual el veintidós coma tres son mujeres si vamos a amurrio

dieciséis coma tres por ciento de paro dieciocho coma nueve por ciento mujeres gasteiz mismo porcentaje dieciséis coma tres por ciento de paro veinte mil personas aproximadamente de las cuales son mujeres oyón veinticuatro coma uno veintiséis coma seis por ciento mujeres y en otros pueblos de la rioja

está claro que en araba desde el comienzo de la crisis se ha producido una sangría constante de destrucción de puestos de trabajo

teníamos un territorio en el que la industria era la base de la economía

del valor añadido bruto en el año dos mil catorce este dato había bajado al treinta y uno por ciento estamos asistiendo a un continuado

a deslocalizaciones de empresas hacia otros países y territorios y además con pocas expectativas de que esta sangría

medidas decididas para la recuperación de la actividad industrial es por eso que compartimos

que fomenten la creación de empleo en araba en especial en aquellas zonas más desfavorecidas y con altas tasas de paro y para ello

necesita un apoyo para su recuperación en forma de inversión

hacer una transición hacia un modelo moderno y cualificado adaptado

de nuestra tierra respetuoso con el medio ambiente energéticamente sostenible y que de pie a la construcción de un modelo económico social solidario

publikoak indartzeko izan behar da y cuando hablamos de desarrollo local sostenible estamos hablando de un sistema de producción que revierte en el desarrollo de los pueblos de las comarcas y cuadrillas un sistema en el que las relaciones económicas y sociales tienen humana un sistema que tiene en cuenta la historia y características del territorio un sistema que prioriza las condiciones de las personas sobre los intereses de las grandes empresas hau da gure iritzia

como ya se ha dicho en las juntas de álava territorio más concernido por el asunto que nos trae hoy aquí y decir brevemente que sean cuales sean las razones que han

de gipuzkoa y al territorio de bizkaia en sus correspondientes zonas desfavorecidas

valle de ayala oyón etcétera y han sido comentadas y

ayudas procedentes de europa sí pero desde un punto de vista de la cohesión y de la vertebración territorial no parece que un territorio que también tiene necesidades no tenga la compensación correspondiente en forma de ayudas públicas para corregir también sus desajustes del mismo modo que van a ser ayudados las zonas desfavorecidas de oarsoaldea en gipuzkoa y margen izquierda

por lo tanto nos parece que era de justicia apoyar esta iniciativa con más razón habiendo sido suscrita por todos los grupos en juntas de araba y por lo demás no tenemos nada más que

como todos ustedes conocen en mayo de dos mil catorce la comisión europea

que permite a las zonas desfavorecidas de europa recibir un diez por ciento más de ayudas

los criterios objetivos para determinar la inclusión en estas zonas fueron determinadas por la unión europea y los estados miembros en nuestro caso el gobierno de españa

dentro de su propia unidad territorial es decir dentro de álava bizkaia y gipuzkoa lo que llaman nivel europeo unidades territoriales estadísticas

españa ha utilizado los indicadores socioeconómicos siguientes renta per cápita tasa de desempleo y evolución en el empleo de la mano de obra y los datos utilizados para estos indicadores fueron extraídos

las estadísticas sobre desempleo son las tasas medias de desempleo para el periodo dos mil diez dos mil doce es decir los tres últimos años para los que se dispone de estos datos publicada

estos son palabras textuales del mapa de ayudas regionales qué ocurre con las zonas desfavorecidas de álava lo mismo que con otras zonas desfavorecidas también de bizkaia y de gipuzkoa que pese a presentarse esta solicitud ante europa de estas zonas no fueron aceptadas por qué

y además de formar esta unidad continua de al menos cincuenta mil habitantes por lo tanto se han quedado fuera con la particularidad de que en álava

debido a que nuestros ayuntamientos son excesivamente pequeños y es imposible conseguir una unidad continua

aprobándose en bizkaia la margen izquierda y zona minera con doscientos ochenta y nueve mil ochocientos veintinueve habitantes y en gipuzkoa la zona de oarsoaldea con ciento sesenta y siete mil seiscientos diecinueve habitantes por eso en nuestra enmienda

para actualizar los criterios de elaboración del mapa de ayudas regionales dos mil catorce dos mil veinte aprobado por la comisión europea

si procede el cumplimiento de los parámetros para la inclusión de álava o alguna de sus zonas como territorio susceptible para recibir ayudas europeas adicionales como territorio desfavorecido y si el partido popular alavés quiere trabajar también en la línea de actualizar estos parámetros para que entre álava o alguna de sus zonas de cara a la unión europea tiene nuestra mano tendida

pondré solamente un ejemplo de cómo se podría haber cambiado estos índices solamente permitiendo que las zonas desfavorecidas permitan una continuidad entre las unidades territoriales de estadísticas es decir los territorios históricos permitiría una zona contigua por todo el corredor natural del río nervión desde la comarca de ayala hasta basauri sin modificar este criterio de los cincuenta mil habitantes que tal vez para la unión europea sea más difícil de modificar con quinientos millónes de habitantes que tiene la unión europea

vemos que euskadi se encuentra comparativamente hablando con mejores índices de empleo de igualdad de cohesión social y de protección social que otras comunidades autónomas

en muchas mejores condiciones que en nuestro entorno más inmediato que es el resto de españa tenemos un magnífico sistema de protección social que junto con el empleo que también es verdad que es de más calidad ha conseguido soportar la crisis económica en mejor medida o con mayor capacidad de resistencia que en otros lugares

en octubre del dos mil quince el número de demandantes de empleo parados registrados en lanbide nos determina que es menor que en enero de dos mil quince hay una disminución de parados a lo largo del año de enero a octubre del dos mil quince

según los demandantes de empleo en lanbide hemos reducido en la comunidad vasca en diecisiete mil quinientos sesenta y seis parados

pero tenemos que tener muy presente que en álava el ochenta por ciento de todos nuestros parados alaveses diecinueve mil setecientos cincuenta y dos

esto es debido a nuestra gran concentración poblacional en vitoria con respecto al territorio alavés

por lo tanto al ayuntamiento de vitoria con el ochenta por ciento de todos los parados alaveses

amurrio con ochocientos dieciocho parados agurain con cuatrocientos cincuenta y uno parado y oion con cuatrocientos nueve parados

esto es a octubre del dos mil quince según las estadísticas de parados de lanbide

estos ayuntamientos no cumplieron los parámetros de la comisión europea para ser incluidos en este mapa de ayudas regionales

esa continuidad y esos índices desfavorables de tal manera que se han quedado fuera votaremos a favor de la enmienda de transacción porque como aquí estamos arrastrando el acuerdo de la diputación alavesa

de la propuesta del partido popular y luego ya votaremos a favor de la enmienda transaccional por el resto de los grupos y creo que es positivo porque en el fondo firme o no el partido popular no está en la misma línea de trabajo entonces creemos que es bueno

especialmente vinculado al desarrollo local de las cuadrillas y municipios afectados asimismo como décimos en el punto dos de la enmienda transaccional instamos al gobierno vasco a explorar otras posibilidades y fuentes de financiación

y ofrecemos también nuestro apoyo tendido para actualizar los criterios de elaboración de este mapa de ayudas regionales dos mil catorce dos mil veinte aprobado por la comisión europea de manera que se justifique si procede el cumplimiento de los parámetros para la inclusión de álava

para recibir ayudas europeas adicionales como territorio desfavorecido

tendida de cara al gobierno de españa para que apoye de manera específica al sector de la máquina herramienta

así como mejorando la coordinación entre diferentes ministerios evitando la desproporción en la indagación de las exportaciones de empresas alavesas también de cara

nuestra mano tendida también para que esta incentivación para el desarrollo económico de álava incluya la apertura durante las veinticuatro horas de nuestro aeropuerto de logística de foronda
así como del puesto de inspección fronteriza eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

me uno al consenso estoy de acuerdo con la transaccional que se ha firmado votaré a favor de ella gracias eskerrik asko maneiro jauna